egun on berriro hoy el grupo mixto y el pse nos traen una proposición no de ley

estafadas por parte de un juzgado y tengan un perfil muy concreto como ahorradores recuperen su dinero

de que sea el ico como ya lo hizo anteriormente quien sostenga esa deuda durante el tiempo que dure el juicio y una vez que la sentencia sea firme pase a cobrarla si bien la idea no nos tiene por qué parecer incorrecta nos parece en parte discriminatoria frente a otros estafados y estafadas por poner un ejemplo

a las que sus ahorros fueron robados por parte de los bancos convirtiendo los ahorros en preferentes y que hoy se enfrentan a juicios contra las entidades bancarias no entendemos por qué no podrían optar a una solución similar además cuando estamos hablando de bancos intervenidos con dinero público y que hoy

ahí el ico podría recuperar el dinero de manera directa y por lo menos se rescatarían personas y no a los bancos este es solo un ejemplo como hay muchos tristemente

beraz arriskua dago diru publikoa izatea iruzurrak ordaintzen dituena como decía tenemos dudas a la hora de aplicar este tipo de soluciones a las estafas que se cometen

de esta manera casi podría decirse que aquellos que cometieron las estafas responderán en caso de que pudiesen únicamente en caso de que pudiesen pero quien respondería siempre sí o sí sería el dinero público por lo que el estafador en definitiva solo sería castigado de una manera contundente siempre que el estado quisiese recuperar la deuda y todos aquí

amigos del poder por lo que difícil veo que no acabe el dinero público pagando todos los trapicheos estafas y desmanes de los de siempre en definitiva y resumiendo

junto con castigos ejemplares contra quienes lo cometen ya que no se puede poner en riesgo el dinero público y hacer que los estafadores no paguen por sus delitos y vuelva a ser la ciudadanía quien tenga que responder con el dinero público que otros se han llevado besterik ez eskerrik asko

mi disertación porque por un lado nos parece una propuesta razonable prudente jurídicamente viable sensata y que parece que puede ayudar

las propias personas que tienen el problema surge la idea por tanto nos parece razonable también

en el congreso de los diputados claro nosotros no estamos ni en murcia ni en canarias y menos en ceuta entonces me refiero a donde estamos y hemos votado a favor

que trabaja sobre un tema donde cuando mandaban uno les reprochaban los otros cuando mandaban los otros se lo reprochaban los unos

están dispuestos a apoyar lo cual ya es un paso adelante simplemente una cuestión

ya más o menos el señor prieto lo ha resuelto a lo largo

ha fallado todo menos la política pero la política también es el parlamento y podían haberlo resuelto

sin saber buscando como las siete diferencias en los periódicos dónde estaba su propuesta y la de upyd he descubierto una coma unas comillas y no sabía realmente lo que tenía que hacer ya

claro que si no se llegaba a un acuerdo íbamos a votar la que primero se presentó que es la del grupo mixto y por tanto la que primero se iba a votar y sin más pues reiterando que apoyaremos

sirva para seguir avanzando en la solución a un montón a miles de personas que

eskerrik asko tellería jauna erantzunen txandara pasatuz mistoa sí gracias presidenta únicamente para agradecer a los grupos su

iniciativas que efectivamente no son de upyd o del grupo socialista sino que son de los propios afectados

lo importante es el consenso y por lo tanto yo me quedo con eso gracias eskerrik asko maneiro jauna prieto jauna zurea da hitza

habiendo tanto de acuerdo parece razonable preservar el acuerdo por encima de todo pero simplemente por hacer algunas puntualizaciones la primera que

salta esto la intervención del gobierno entonces lo que hizo fue dos cosas la primera tratar de que no aumentara más la estafa porque

y que llevaba muchos años y que se intentaba que no continuara en segundo lugar se pretendió entrar en una fase concursal para que se devolviera

empleado es cierto que eso no ha funcionado es cierto que desde entonces se ha recuperado muy poco dinero que además el proceso concursal

y es cierto que se tomaron algunas medidas complementarias que tampoco resolvían el problema ya en el año dos mil siete se planteó

que además eran créditos sin interés sin embargo por ejemplo después se han prorrogado con otro gobierno y se han prorrogado por dos años con un interés del tres coma cinco por ciento para tratar de paliar

yo he planteado aquí con toda sinceridad lo he dicho al principio que la política ha fallado y cuando la política ha fallado y el partido socialista

es evidente que se encuentra afectado por esos fallos pero no el único mire

también así con la amabilidad y cordialidad como usted lo ha hecho conmigo una cosa que pasó

y la misma pasó el veintidós de febrero del mismo año a los afectados se les manda una carta en las que

promoveremos la constitución de un fondo de garantía para cubrir los perjuicios ocasionados por los inversores en activos tangibles después se le dice que crearemos una línea de créditos

sin intereses y con una duración equivalente a la resolución del proceso concursal y de los procedimientos judiciales y también se les dice incrementaremos todos los medios humanos

y el resto de procedimientos judiciales esto se firma el once de febrero del dos mil ocho

y los firmantes son dos personas que probablemente usted desconocerá una miguel arias cañete y la otra mariano rajoy

de esas cartas y del programa del partido popular que lo que decía es que nosotros sí cumpliremos la ley

el partido socialista dijo aquí no hay crisis esto es fantástico de los nervios y ganaron ustedes las elecciones y por lo tanto no se pudieron cumplir esas cartas y luego con la inestimable ayuda del partido nacionalista vasco que sale aquí diciendo bueno esto es cosa de unos los otros no sé qué oiga ustedes

le votaron todo le aprobaron todo y le apoyaron en todo no venga aquí diciendo no nosotros aquí pasábamos

con los del partido nacionalista vasco y con los del partido socialista en cualquier caso yo me sumo a que todos estamos de acuerdo ahora

pero también le digo al señor prieto que efectivamente es muy posible que había que detener esa estafa

intentando salvar a los estafados que es lo que no se hizo y es lo que ahora intentamos hacer entre todos o por lo menos algunos

semanas formulamos una interpelación al gobierno en relación

correspondiente a las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral previstas en los apartados a b y

sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral viendo claramente que la intención de este gobierno es no ampliar

y que no ha sido suficiente para satisfacer todas las solicitudes hemos considerado absolutamente oportuno presentar esta proposición no de ley que la presentamos también en su momento con una doble intención por una parte instamos al ejecutivo al gobierno vasco a que amplíe

dos mil catorce y que ya de cara al próximo ejercicio y como se están elaborando los presupuestos por parte del ejecutivo se habilite una partida con la cuantía económica necesaria para

que se puedan formular porque sabemos por la

donde se hizo público el agotamiento del crédito presupuestado consignado

la concesión de estas ayudas nosotros hace dos semanas también denunciamos claramente la falta de voluntad política de este

se pueden dotar o ampliar económicamente pero es que en este caso creemos que se evidencia de forma más clara la voluntad de este gobierno

formuladas porque hay una previsión en el punto catorce del anexo de los presupuestos en donde se dice que estas partidas son créditos ampliables como lo son por ejemplo también las ayudas correspondientes a la

de vivienda es decir estas ayudas dentro del anexo de presupuestos en su punto catorce hay una previsión de que sean créditos ampliables por lo tanto

el propio gobierno se podría decir así está incumpliendo su propia ley de presupuestos y su propio anexo que estipula

créditos ampliables consideramos que también la ley de apoyo a las familias

habla de un objetivo claro de crear las condiciones o remover los obstáculos para que las parejas puedan tener los hijos hijas que deseen y para ello establecen

con el fin de que las familias con hijos a cargo puedan alcanzar la convergencia en el horizonte del dos mil veinte en ese sentido como decía anteriormente se presupuestó dentro del programa hiru mila ehun eta hogeita laupolítica familiar y comunitaria una partida por diecisiete

que claramente ha resultado insuficiente también hay que decir que esta partida se ha recortado

era de treinta y cinco millónes de euros y que las solicitudes formuladas a partir del veintiocho defebrero no se van a atender este año y tal y como se nos dijo el consejero serán con los presupuestos del ejercicio que viene

afirmación y como digo evidencia y pone de manifiesto una falta de compromiso

de conciliación y porque además como he dicho hay herramientas para hacerlo y no nos vale el argumento de decir que se deja para el año que viene porque cuando una familia solicita ayudas para la conciliación se supone que quiere programar su vida familiar

que quiere organizarse y por lo tanto las ayudas las está solicitando para un momento puntual y determinado y a parte que el año que viene nos volveremos a encontrar con el mismo problema

del año que viene no podrán ser atendidas en ese momento y tendrán que demorarse o

o atendidas en un futuro pero como decía creemos que estamos ante un nuevo recorte

pero es un claro recorte en la política social en la política familiar en la política de conciliación que perjudica a las familias vascas y además en un momento de crisis económica en el que las familias lo están pasando mal y por lo tanto creemos que es una herramienta

para poder ayudar a las familias como digo en un momento de especiales dificultades a parte que también estas políticas desde luego nosotros creemos que sirven para afianzar todas las políticas de empleo y sobre todo las políticas de empleo que van dirigidas

como son las mujeres ya se nos ha respondido también en una respuesta formulada

de año desde enero de dos mil catorce hasta la fecha por lo tanto

que no tienen una solución a unas ayudas concretas que han solicitado y por lo tanto

aunque sea con retraso no vale esa respuesta señor consejero y creo que tampoco no le vale al partido popular no le vale a las

de que sus solicitudes se resuelvan de acuerdo a una ayuda

prevista en la legislación vigente en el decreto al que he señalado y que estaba además presupuestado en los presupuestos eso sí de forma insuficiente y que ustedes no han querido dotarla

económica creemos que esta decisión desde luego agrava claramente la situación económica y social

penaliza a uno de los sectores también que son más vulnerables en el mercado de trabajo como son las mujeres por lo tanto constatamos una falta de voluntad política de este gobierno que la política social no está entre las prioridades de este gobierno y por qué no se amplia esta partida señor consejero

que el escenario ya previsto de la recaudación para el ejercicio siguiente o que el escenario presupuestario es mejor del que nos imaginábamos por qué no se amplia esta partida cuando estamos conociendo estos días

ha recuperado la cantidad de ochocientos cincuenta mil euros por los cobros indebidos mejor dicho pagos indebidos es decir

de una forma clara que hay una falta absoluta de voluntad política de este gobierno porque yo le hago la pregunta muy concretamente si ustedes ahora están sacando pecho todas estas semanas de que los de los famosos pagos indebidos han recuperado esa cantidad

toda ella incluso la que vayan a seguir recuperando porque así además lo ha dicho el consejero que tienen intención de recuperar

las ayudas que estas familias están esperando y que no llegan para concluir para el partido popular se ha cerrado el grifo

se les ha escapado y demuestra el compromiso claro de este gobierno como digo con la política social

la boca y en declaraciones por activa y por pasiva nos dice que la solidaridad es uno de los valores de este pueblo

que más lo pueden necesitar o también este gobierno

al principio de esta legislatura que el centro eran las personas pues cuando llega el momento de la verdad a las familias vascas se las deja claramente olvidadas desde luego se trata de establecer prioridades y para el partido popular

afianzar el estado de bienestar es una prioridad y lo que vemos claramente es que no están entre las prioridades de este gobierno por todo ello presentamos una

la dotación económica prevista para los presupuestos de este año que claramente ha resultado insuficiente y un compromiso del ejecutivo con incrementar esa

que el ejercicio que viene los presupuestos del año que viene se dote adecuadamente esa partida y sobre todo viendo

y que ha sido claramente insuficiente vamos a apoyar una enmienda de transacción por entender que recoge claramente

que planteamos y que acabo de explicar y por lo tanto daremos el voto favorable

estábamos de acuerdo con las iniciativas originales planteadas y también estamos de acuerdo con lo que finalmente se ha recogido en esa enmienda de transacción

el grupo popular estamos toda la oposición por lo tanto de acuerdo en lo que ahí se propone más allá de que hayamos presentado una enmienda pues lo cierto es que ya digo que

transaccional que se ha firmado nosotros evidentemente estamos de acuerdo con que este parlamento manifieste su rechazo a este nuevo recorte impulsado

estamos de acuerdo en que tenemos que instar al gobierno a ampliar la partida prevista para las ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral

cumplirse el plazo de resolución y notificación de las solicitudes previsto en la ley sobre ayudas para la conciliación de la vida laboral

en que hay que incrementar en los presupuestos del próximo ejercicio las ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral para dar respuesta a todas las solicitudes que cumplan sus condiciones y estamos también de acuerdo en que tenemos que instar al gobierno que analice

que en un futuro los mecanismos que hagan posible una conciliación eficaz entre la vida laboral y las obligaciones de cuidados a mayores menores o personas con distintos tipos de dependencia para alcanzar tan pronto como sea posible el nivel de las políticas públicas europeas estamos totalmente de acuerdo por lo tanto pues lo que se dice en la transaccional firmada

de esos que no impulsa el gobierno vasco en el uso de sus competencias es un nuevo por lo tanto recorte social impulsado voluntariamente por parte del gobierno vasco primero se rebajan las cuantías presupuestarias

denunciamos en su momento luego se decide no ampliar la exigua

en los presupuestos y además las ayudas que se pagan se pagan tarde por lo tanto volvemos a estar ante un nuevo recorte social voluntariamente por este gobierno sin que en este caso el gobierno de españa tenga nada que ver por lo tanto volvemos a estar de nuevo ante un caso de falta de voluntad

de falta de recursos pero recursos hay lo que pasa es que se trata de destinar los recursos a realmente

marcar las prioridades y para nosotros pues está sería una de las prioridades es necesario que las personas

las ayudas con las que cuentan es necesario que gocen de estabilidad para reducir su riesgo de exclusión y para poder diseñar un plan de vida que les ayude a mejorar su situación

definitiva que se haga lo que dice la enmienda que debe hacerse por lo tanto en este caso otra vez pues estamos de acuerdo toda la oposición

todos los grupos de la oposición pues sean beligerantes en cuestiones tan sensibles como esta nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias presidenta buenos días señorías intervengo en este parlamento en representación del grupo socialistas vascos con el fin de debatir las proposiciones no de ley presentadas por el grupo eh bildu y el grupo popular relativa

así como defender en su lugar la enmienda transaccional acordada entre mi grupo parlamentario y el grupo eh bildu y que

por el grupo popular aunque coincidía con todos sus planteamientos pero espero que como ha manifestado la representante del grupo popular voten a favor de la misma porque coincide enormemente con lo ellos presentaron señorías hoy me hubiera gustado

a las afectadas por la plataforma de ayudas

pero no han podido estar hoy aquí con todos nosotros porque tenían previsto que probablemente este punto se debatiría esta tarde y al ser adelantado a la mañana

el poder recoger a sus hijos ahora mismo del colegio con estar aquí con nosotros en el parlamento señorías faltando cinco meses para que acabara el año se agotó ya el dinero con el que contaba el departamento de empleo y políticas sociales

a las ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar en concreto se agotó

esta situación va a poner en serias dificultades la posibilidad de conciliar la vida laboral con su vida familiar hasta finales de año a cerca de entre diez mil o doce mil familias afectadas pero es que además no solo se ha agotado el dinero en agosto sino que además solo se han pagado hasta septiembre las cantidades de las solicitudes presentadas por los ciudadanos hasta de este año y además este año se empeora la situación que se produjo en el año dos mil trece donde las partidas presupuestarias se agotaron

de noviembre para estas ayudas es importante destacar que estos recortes en gasto social perjudican fundamentalmente a las mujeres que son

supone una dificultad añadida a la conciliación siendo esta una condición necesaria para poder reducir desigualdades y fomentar la igualdad

el pasado veintidós de agosto una resolución donde se consignaba que se había agotado todo el crédito presupuestario para este año para estas ayudas pero esta situación era previsible dado que el gobierno vasco había habilitado este año solo diecisiete coma tres millónes de euros para la partida de conciliación la mitad de la dotación presupuestaria

que destinó el anterior ejecutivo socialista a estas ayudas los número cantan en el año dos mil diez se aumentó esta partida hasta treinta y cinco coma dos millónes de euros

se destinaron treinta y cuatro coma uno millónes de euros y en el dos mil doce se destinaron treinta millónes de euros sin embargo el gobierno de urkullu la dejó en diecisiete coma tres millónes de euros para el ejercicio dos mil trece y dos mil catorce durante el ejercicio dos mil trece no se realizó

por considerar que esto no era necesario a pesar de que se había agotado también

llegamos al dos mil catorce y sabiendo que se habían agotado el año anterior en noviembre

para tener que ser aprobadas en el primer trimestre del dos mil catorce no ampliaron ustedes las partidas destinadas a facilitar la conciliación para este año siendo esta fundamental para muchas mujeres para hacer posible económicamente que muchasmujeres puedan seguir trabajando y cotizando aunque sea

con contratos precarios o con sueldos bajos esto qué ha ocasionado

se ha agotado en agosto cinco meses antes de que termine el año

si el plazo medio de resolución de expedientes en el dos mil doce era de ochenta y siete días en el dos mil catorce el plazo medio de resolución

y ciento ochenta días si seguimos así saltaremos del tiempo máximo de seis meses

esta es la situación que se ha generado con los recortes que en estos dos últimos años

del actual gobierno vasco a las partidas de ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar además hay que tener en cuenta que sigue siendo una realidad que son las mujeres las que siguen asumiendo la carga fundamental de la conciliación en las familias las más afectadas por este recorte en gasto social entonces por qué no han adoptado medidas para acabar con esta situación este gobierno se preocupa

queremos apostar realmente por la conciliación fundamental para muchas mujeres

este año se ha aumentado la recaudación fiscal como consecuencia de la reforma fiscal que ha sido posible gracias al acuerdo

y el grupo socialista el gobierno vasco cuenta por tanto con recursos por ello

es porque simplemente no quieren destinen parte de estos recursos

de poder facilitar la conciliación a las personas afectadas y además háganlo ya estamos hablando de cantidades fundamentales para muchas mujeres yo he estado con ellas estamos hablando por ejemplo de mujeres afectadas solteras con dos

para poder pagar las guarderías estamos hablando de mujeres que gracias a esta ayuda pueden apostar por mantener su trabajo aunque los ingresos que perciben con este trabajo apenas cubran los costes que suponga llevar a sus hijos a las guarderías o contratar a alguien para cuidarlos mientras ellas trabajan

quieren seguir trabajando quieren seguir teniendo una carrera profesional y cotizar de cara a prestaciones futuras estas familias cuando optaron por la excedencia por la reducción de la jornada o decidieron contratar a alguien contaban con este dinero que ahora van a dejar de percibir pero además de ampliar la partida este año también es importante tenerlo

para los presupuestos del año que viene de no corregirlo puede suponer que muchas mujeres afectadas tengan que dejar de trabajar o despidan a la persona que está cuidando de sus hijos

por no poder asumir ese gasto si se le retrasan las ayudas porque las necesitan ahora no en marzo del año que viene si creemos realmente en el valor de la igualdad entre mujeres y hombres tenemos

si no también de facilitar los mecanismos de acceso y disfrute efectivo a los mismos dando así el paso definitivo

a la igualdad real y efectiva por eso defiendo hoy la enmienda transaccional que hemos firmado entre el partido socialista

eh bildu porque defiende la ampliación presupuestaria para este año dando satisfacción a todas las solicitudes

porque insta al gobierno vasco a incrementar esas partidas en el presupuesto del año que viene porque también le insta a cumplir

del decreto veintinueve de junio del dos mil diez que en ningún caso podrán pasar de esos seis meses y también

en este ámbito existen enormes dificultades se analicen profundicen y desarrollen las medidas que puedan garantizar en un futuro mecanismos para tener una conciliación eficaz entre la vida laboral y las obligaciones de cuidados de mayores menores o personas con distintos tipos de dependencia el problema de la igualdad hoy no es de regulación ni de reconocimiento pero sí de aplicación

hagamos lo posible por eso le pido a todos los grupos parlamentarios el apoyo a esta enmienda transaccional que permite conciliar su vida laboral y familiar
a muchas mujeres a muchas familias que lo necesitan en estos momentos nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

guztiz garrantzitsuak direlako gaia ondo kokatzeko las ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar no han sido eliminadas

sigue en vigor por lo tanto por mucho que repitan los portavoces que dichas ayudas han desaparecido no es cierto el decreto que las regula continúa en vigor tal y como decía el consejero aburto

la partida habilitada en dos mil catorce para este fin se ha agotado por lo que han cesado los pagos no la vigencia del decreto insisto y han cesado

o bien hasta que se apruebe el próximo presupuesto además dejó claro su compromiso de destinar a ayudas a la conciliación cualquier remanente de ahorros del departamento en caso de que se dieran tal y como el año pasado ocurrió y que fueron destinados a ayudas de emergencia social

indarrean mantentzen dituenak respecto a la ampliación de la partida

en el pleno de control que era una partida ampliable según el presupuesto en vigor porque usted insistió hasta la saciedad en esta cuestión que será ampliable solamente quiere decir que se podrá ampliar si hay disponibilidad si hay recursos y lo cual no ocurre desgraciadamente y no se trata de una cuestión de voluntad política sino de disponibilidad presupuestaria este gobierno se ha comprometido a no gastar más de lo que tiene y le recuerdo también hoy como ya se hizo el pasado día tres que no ha sido el que modificó la constitución de un día para otro para contener el déficit de esa manera tan profunda y lo ha explicado muy bien la señora gorospe en el punto

los recursos limitados del departamento se han destinado en primer lugar a abonar las cantidades contempladas como derecho subjetivo en la legislación

y las ayudas para la conciliación no lo son como ustedes conocen muy bien además

puedan llevar a cabo políticas adecuadas para la conciliación de la vida laboral y familiar de sus empleados lo cual corrobora el compromiso de este gobierno y del grupo que lo sustenta

familiar y laboral estas ayudas a las empresas son

al que se destinan algo más de dos millónes de euros un noventa por ciento de estas ayudas son solicitadas por mujeres como han dicho también otras portavoces los cuidados siguen recayendo primordialmente en las mujeres por lo que no compartimos la postura de la representante del partido popular en este apartado el hecho de que se hayan suspendido no es la causa de que las mujeres salgan del mercado laboral quizás es justamente lo contrario puesto que son ellas las que solicitan este tipo de ayudas

y supongo señora garrido que cuando habla de estas ayudas de la solicitud de estas ayudas para todas las mujeres también las estará solicitando para las personas inmigrantes y también para aquellas que incluso no hayan cotizado

iniciativa original de eh bildu no estamos de acuerdo con lo solicitado en el apartado primero puesto que negamos la mayor no se ha producido un recorte el decreto de ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral sigue en vigor aunque se ha retrasado el abono de las mismas

respecto al apartado segundo de su iniciativa tal y como le explicaba a la señora garrido la partida es ampliable si hay disponibilidad presupuestaria lo cual reitero desgraciadamente no se da

el punto primero de upyd partido popular y partido socialista porque piden exactamente lo mismo en las iniciativas originales el punto tercero de upyd precisamente pretende la supresión del artículo cincuenta y tres punto dos del decreto ciento setenta y siete barra dos mil diez que es

a denegar la concesión de ayudas en el supuesto de que el presupuesto al que deban de imputarse carezca de crédito adecuado y suficiente para la finalidad pretendida

no estamos de acuerdo con la supresión de dicho apartado que insisto una vez más permite la suspensión de la concesión de ayudas retrasando su pago a nueva disponibilidad presupuestaria y continuando en vigor la eficacia del decreto en cuanto al punto tercero

entendemos que no es el momento para ello máxime cuando queda

el proyecto que ustedes podrán aprobar enmendar o lo que estimen pertinente vistas las partidas reflejadas para cada concepto

en este mismo sentido son los apartados segundo de upyd partido popular y partido socialista todos han coincidido

compartimos con bildu la necesidad de profundizar y desarrollar medidas en el ámbito de la conciliación

tendiendo nuestra mano para abordar la sostenibilidad de nuestro sistema de protección social donde creemos que podríamos también abordar la problemática concreta y dificultades que conlleva la conciliación de la vida familiar y laboral norberaren bizitza eta enplegua uztartzeko egunerokotasunean dauden zailtasunak izugarriak

azken puntu hau onartzeko prest gaude ikertzeko sakontzeko eta denon artean adostasunetara heltzeko como se dijo en el pasado pleno de control euskadi tiene un problema estructural y requiere de medidas para afrontar de verdad el problema del envejecimiento y los bajísimos índices de natalidad para ello es necesario un proceso de reflexión de largo recorrido y que dejará aprobado para el final de esta legislatura una estrategia consensuada

es una clara apuesta tanto de nuestro grupo como del gobierno vasco para solucionar la problemática surgida respecto a estas ayudas de conciliación y que esperemos

por último y porque creemos que toda medida encaminada a favorecer la conciliación familiar y laboral es necesaria nos vamos a abstener a la enmiendatransaccional acordada entre eh bildu y partido socialista que suponemos como ya han anunciado que también apoyaran el partido popular y upyd aunque se hayan negado o no hayan firmado por

lasaitasunera ez du eramaten reitero falta de voluntad política absoluta de este gobierno yo creo que se están escudando con el tema

de la disponibilidad presupuestaria vuelvo a repetir

es un derecho subjetivo pero es ampliable y es un crédito ampliable porque viene

en el punto trece del anexo de presupuestos como un crédito ampliable igual pasa con las ayudas a conciliación que van en el punto catorce por lo tanto aquellos créditos que son ampliables entre unos cuantos son estos dos

prestación complementaria de vivienda y las ayudas a la conciliación si lo son es porque aparecen como previsión dentro de las partidas que pueden ser ampliables por lo tanto

las propias previsiones de la ley de presupuestos

de empleo y asuntos sociales que está aquí en esta sesión parlamentaria

uno se tiene que apretar el cinturón y esto es lo mismo que le puede pasar a cualquier

y es lo que tiene que hacer cualquier administración pública en estos momentos es priorizar y lo que ha quedado patente y claro y de manifiesto

es que no hay una voluntad y que la política social no es una prioridad de este gobierno

y es cuando se ven realmente dónde están las prioridades de un gobierno y en este caso se ha visto claramente que la política social la política de conciliación y la política de la familia no es una prioridad de este gobierno

de acuerdo a las prioridades pues miren ustedes dónde hay despilfarro dónde se malgasta el dinero público dónde se puede recortar en sociedades públicas en altos cargos si yo creo que no es tan difícil pero ustedes lo que han dejado es abandonadas a las familias vascas y desde luego esta decisión creemos

puede agravar y de hecho agrava la situación de estas familias es que en momentos de crisis económicas precisamente lo que hay que

proteger es a las familias y a las personas que lo están pasando mal por lo tanto creo que es una decisión que es muy perjudicial para las familias para las familias que además están pasando

con la crisis económica en estas circunstancias y vemos que a la hora de la verdad a las familias vascas se las deja abandonadas o sea se las deja totalmente

y esperemos que como hay un mandato claro y el partido que apoya este gobierno y este gobierno

a abstener hay un mandato claro de que en dos direcciones y en dos

de este año que ha sido claramente insuficiente que ya fue recortada la mitad

los presupuestos yo creo que es algo muy oportuno decirlo en estos momentos pues consignen aquella cantidad
que estimen que va a ser las necesarias para cubrir las solicitudes que puedan besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea maneiro jaunak ez du hitzik hartu behar

no vale con pagar las ayudas de conciliación de la vida laboral y familiar el año que viene ya sé que no se han suprimido

no les basta con que se les diga que solo se suspenden y que se les pagará

le he puesto ejemplos de que pueden generar muchos problemas desde este momento a las mujeres afectadas y a las familias afectadas porque no van a poder aguantar a lo mejor muchas de ellas el retraso de

es ampliable amplíenla sin el compromiso de la actuación pública

los avances definitivos en materia de igualdad entre hombres y mujeres y es muy peligroso

de oportunidades porque sin duda tendrá efectos no solo sobre las personas sino sobre la calidad de la actuación pública sobre la prevención de la discriminación

hacen que la pobreza afecte de manera especial a las mujeres las mujeres son mayoría entre las perceptoras de salarios y pensiones más bajas

en la mayoría entre la población beneficiaria de los servicios sociales

un modelo que además puede suponer graves retrocesos si se produce la retirada o los retrasos como se están produciendo de apoyo a las familias

y con ello empeorara las oportunidades de autonomía y el ejercicio de los derechos de las mujeres y no podemos olvidar el contexto en el que nos movemos

ha conseguido devaluar los salarios abaratar y facilitar el despido incrementar el poder de los empresarios y las empresarias en la gestión de las condiciones de trabajo y

está reduciendo mucho el ejercicio del derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar y está expulsando a muchas mujeres del mercado laboral

a trabajos a tiempo parcial o de dedicación marginal si a esto le añadimos que se le van a producir un retraso en las ayudas

laboral y familiar las dificultades son aun mayores los socialistas vascos seguiremos en la lucha contra la desigualdad ya que creemos firmemente

sobre las mujeres la calidad de nuestro sistema se puede medir por la consolidación de los derechos de la ciudadanía y con independencia de que podamos debatir para consolidarlo en el futuro ahora es prioritario y lo que toca es que las familias que necesitan estas ayudas para conciliar su vida laboral y familiar cuenten con ellas este año y el que viene reitero por tanto

y el grupo eh bildu y espero

manifestado aquí voten a favor de la misma el grupo popular

es horade demostrar si se cree realmente en las personas

cree realmente en la conciliación de la vida familiar y laboral no caben excusas llevamos dos años de recortes en estas ayudas y la pelota cada vez se hace más grande se ha recaudado más este año lo hemos señalado ya amplíese

laboral y familiar y aumenten la partida para el año que viene dedicada

en el presupuesto del año dos mil quince espero que cumplan con lo que hoy probablemente será aprobado con el voto a favor

y la abstención del grupo nacionalista vasco porque si no lo hacen estarán demostrando que el gobierno vasco actual no quiere apostar

ez dutela kobratuko ze hori ez da egia a la señora garrido insistir en que es ampliable si hay disponibilidad presupuestaria y creo que no me ha escuchado en la primera intervención

del decreto doscientos setenta y siete del dos mil diez que es el que regula las ayudas

por lo tanto se está haciendo con absoluta cobertura legal señora garrido usted hablaba que no estábamos cumpliendo el presupuesto estamos cumpliendo la normativa específica que es el decreto al respecto también ha dicho en las épocas de crisis económica hay que proteger a las personas sobre todo a las que lo están pasando mal y le pregunto

tampoco me ha respondido no sé si no me ha escuchado es a todas las personas a las inmigrantes a las que llevan menos de diez años empadronadas a las que hayan cotizado

a todas las personas quiere usted otorgarles ayudas de conciliación ya se lo he preguntando en la primera pero cómo no me ha contestado pues ahora he tenido que volver a sacar este tema a ver si en alguna otra ocasión

contestar y respecto al partido socialista la señora sánchez decirle que ahora entiendo por qué esa insistencia suya en el apartado de su enmienda inicial y que después también la han

respecto al cumplimiento en el plazo de seis meses en la resolución de las ayudas porque este gobierno

hasta que se ha paralizado el abono de las ayudas

lo cual no ocurría cuando ustedes el partido socialista tenían responsabilidades de gobierno

en meter ese apartado de cumplimiento en los seis meses y también para finalizar decirle que el gobierno está trabajando en esta materia

se puedan solucionar todas las peticiones a la mayor brevedad besterik ez eskerrik asko eskerrik asko arregi andrea

que presentamos hoy aquí los socialistas vascos se basa en un fundamento que creo es fácil de explicar el objetivo de la misma es el de hacer justicia con un colectivo

antes que los miembros de las policías locales colectivos con condiciones de trabajo equiparables a las de estos que se vean reconocidos derechos profesionales como los factores de peligrosidad y penosidad asociados al desempeño de la actividad y el anticipo de la edad de jubilación por lo tanto insisto es el momento de hacer justicia con nuestros policías locales como antes se hizo con los bomberos o con la ertzaintza por ejemplo el real decreto trescientos ochenta y tres barra dos mil ocho de catorce de marzo

sea a los sesenta años así mismo en dos mil nueve se aprobó en el congreso de los diputados unas medidas que modificaban la ley cuarenta barra dos mil siete de cuatro de diciembre que permitía la aplicación de los coeficientes correctores en la edad de jubilación

esto es lo que pedimos que se haga para todos los policías locales del estado cuando hablo de hacer justicia estoy queriendo decir que la actividad y funciones desarrolladas

no se diferencia en las principales materias de seguridad que afectan a la ciudadanía de las actuaciones realizadas por los cuerpos de policía integrales como en nuestro territorio

que como ya hemos dicho han visto reconocido el derecho al anticipo de la edad de jubilación por lo tanto no parece sustentarse en ninguna lógica

que conforman la policía vasca y que se ven sujetos a una misma regulación legislativa en todos esos aspectos se excluya de ellos el de la edad de jubilación

que los requisitos psicofísicos precisos para el correcto desempeño de esta actividad no son alcanzables a partir de una determinada edad la proposición que presentamos hoy quiere que se reconozcan los derechos de un colectivo determinado pero por nuestra parte tienen un objetivo añadido

de un mejor servicio público no creo que sea difícil de comprender que el rejuvenecimiento de las plantillas

se mejora la atención a los ciudadanos y se reducen los índices de absentismo por motivos de salud los socialistas apoyamos que se adelante la edad de jubilación de los policías locales porque entre otras cosas puede ser una forma de generar empleo público se calcula que a nivel estatal en el primer año de aplicación

que lejos de ser amortizadas deberían ser cubiertas por las correspondientes ofertas públicas de empleo incluso si nos detenemos en el aspecto económico esta medida

de antigüedad y trienios también desde el punto de vista comparativo es una medida recomendable en otros países de la comunidad europea como alemania

la edad de jubilación de los policías locales está establecida entre los cincuenta y cinco y los sesenta años soporte legislativo existe

ya se han establecido las mismas medidas para otros colectivos por otra parte consideramos una exigencia que para que se regulen todos estos casos la relación de un catálogo de enfermedades profesionales que tenga en cuenta las condiciones de

que tenga por objetivo reconocer las profesiones de riesgo entre las cuales debe ser incluida la profesión de policía local conclusión pedimos a las instancias competentes

que se está dando en relación con los policías locales hemos llegado a una enmienda de transacción entre mi grupo y los otros dos grupos enmendantes eh bildu y partido nacionalista vasco

por una parte se insta al gobierno de españa a que inicie la tramitación para la aplicación de los coeficientes reductores en la edad de jubilación a los miembros de las policías municipales

en un segundo punto instamos también al gobierno de españa a que modifique

en lo que afecta a los policías locales de todo el estado y por último solicitamos también al gobierno de españa la relación de ese catálogo al que me he referido de enfermedades profesionales para que se pueda reconocer las enfermedades adscritas

y que se reconozcan como profesiones de riesgo y también a otras profesiones que pueden ser añadidas a ello bien agradezco a los portavoces de los grupos enmendantes la disposición para llegar a acuerdos

y solicito de los grupos no enmendantes el apoyo a esta enmienda que como digo no tiene más objetivo que acabar con una discriminación que se produce con los policías locales

iniciativa se ha planteado desde las distintas secciones sindicales de las policías locales en concreto la propuesta inicial del grupo socialista hacía referencia

y nuestro grupo el grupo nacionalista enmendó dicha propuesta con otra propuesta de otro sindicato en concreto el sindicato ela que básicamente

la propuesta del grupo nacionalista hacía referencia a las policías locales del país vasco siendo conscientes de que también tiene una afectación o debiera tener una afectación a todos los policías locales del estado

patente y constatado en las negociaciones que se llevaron entre el grupo vasco y el partido socialista en el dos mil nueve de cara a la aplicación de la jubilación anticipada a los miembros de la ertzaintza y también otro matiz importante era que nuestra propuesta planteaba como sí creo que se ha recogido o se puede interpretar de la enmienda transaccional

mediante un real decreto y no a través de una iniciativa instando al congreso de los diputados que dado las fechas en las que nos encontramos y lo que una tramitación parlamentaria de este tipo conllevaría podía conllevarnos a una iniciativa que iba a quedar por el camino entonces

que hoy podemos recoger aquí y que sea recogido en otras instituciones si hay voluntad política pues esta modificación legislativa se haga a través de un real decreto lo cual permitiría que los tiempos

pudiera dar cumplimiento a esta propuesta este tema también ha sido tratado en diversas instituciones de euskadi y del estado español

a las capitales ha sido aprobado tanto una como otra de estos planteamientos sindicales en las capitales en bilbao en gasteiz en donostia y haciendo una referencia también a basauri getxo

y por volumen de población y de policía municipal pues en todas ellas ha sido aprobado por unanimidad en esas en concreto en esas

aprobado por unanimidad de los concejales de esas corporaciones

la mayor totalidad salvo upyd estamos aquí representados en esta cámara

es por ello que creo que ha sido fácil y así se ha puesto de manifiesto anteriormente llegar a una enmienda transaccional con el grupo socialista proponente y eh bildu que esperamos sea respaldada también por el resto de grupos de esta cámara y que básicamente como decían

el uso de la palabra se resume en dos puntos en primer lugar instar al gobierno español que es el competente actualmente en tanto en cuanto

a la transferencia la competencia en materia de seguridad social a que proceda a la tramitación necesaria para la aplicación de coeficientes reductores

y decíamos que instábamos a que se haga mediante real decreto

y por otro lado y enlazando con lo anterior solicitar al gobierno español el reconocimiento del riesgo de la profesión policial y un catálogo de enfermedades profesionales que no estaba punto este que no estaba recogido en nuestra enmienda de totalidad pero que creemos que mejora la propuesta final la ley vasca de policías señala

y como se ha mencionado desde el año dos mil diez mediante un acuerdo del grupo vasco y el socialista en las cortes generales los miembros de la ertzaintza se pueden jubilar anticipadamente a los sesenta años

como en la mayor parte de los países europeos al que se hacía referencia también anteriormente

desde el año dos mil ocho puede jubilarse también a los sesenta años por tanto a nuestro grupo nos parece adecuado y justo el planteamiento de que la policía local se incluya como profesión de naturaleza especialmente penosa toxica peligrosa e insalubre tal y como señala el artículo ciento sesenta y uno

al margen de otros aspectos que aquí también se han mencionado como pueden ser

económicas y sobre todo también de mejora de la seguridad ciudadana lógicamente esta inclusión va a conllevar el establecimiento de unos coeficientes reductores

y será necesario realizar los ajustes necesarios en la cotización para garantizar el equilibrio financiero estos ajustes serán sufragados

en las que prestan servicio viendo incrementadas sus respectivas retenciones

tendrá otras compensaciones directas e indirectas que entendemos que son muy favorables para el colectivo y para la sociedad y por tanto nuestro grupo

tanto la original como la transaccional lógica justa y razonable

con nuestro voto de hecho upyd ya presentó hace algunos meses una proposición no de ley en el congreso

en la edad de jubilación de los policías locales esta iniciativa que se debatirá creo que

dos cosas por un lado reconocer la profesión de policía local como profesión de riesgo poniendo en fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta ni la siniestralidad

para el desarrollo de la labor policial y por otro lado incorporar el colectivo de policías locales a los grupos profesionales a los que se aplican coeficientes reductores

esta iniciativa se registró algunos meses en el congreso de los diputados y por lo que me cuentan se va a debatir en breve en la comisión de empleo y seguridad social del propio congreso esperamos que la unanimidad que pueda haber aquí en relación a esta cuestión

en el congreso de los diputados los argumentos ya han sido explicados por los diferentes grupos son creo que bastante claro no hay demasiadas la actividad desarrollada por los policías locales cumple los requisitos para ser considerada especialmente peligrosa y arriesgada otros países de nuestro en torno también se ha dicho

consideran teniéndolo en cuenta en las condiciones de jubilación en la mayor parte de los países europeos los agentes de la policía local se jubilan entre los cincuenta y cinco y los sesenta años y tal y como se ha dicho también hay precedentes en nuestro propio por lo tanto una iniciativa justa para los propios afectados o para los directamente afectados para los agentes y positiva también para de la sociedad y que además acaba con una discriminación injustificable por eso nos parece correcta tanto la iniciativa original como la transaccional que finalmente

a todos y buenas tardes también a los portavoces de las policías municipales y locales que están aquí yo

de alusión como un trabajo especial a la policía municipal yo sí quiero

esa alusión creo que es preciso igual que hacemos el reconocimiento a otras policías que es preciso hacer un reconocimiento a las policías locales

de la policía desde luego si hay una policía que es profesional una policía que es capaz pero sobre todo una policía que es cercana que es próxima esa es la policía local la policía municipal una que antes de estar aquí ha estado en un ayuntamiento sabe que

de los problemas que la ciudadanía tiene en los municipios en muchas ocasiones llega a donde tiene que llegar gracias a la policía municipal y a su trabajo por lo tanto creo que no solamente porque

está el servicio de la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos sino como decía

merecen el reconocimiento y por lo tanto merecen que no haya discriminaciones como hasta ahora ha habido la verdad es que hablar en último lugar pues lo que hace es que lo que una vaya a decir ya se ha repetido aquí pero creo que

a fin de que se vea que la posturas de todos los grupos son unánimes y van en el mismo sentido

y una reivindicación a juicio de este grupo absolutamente

tal y como se ha señalado aquí es verdad en otras comunidades autónomas en numerosos ayuntamientos de nuestra comunidad y de otras comunidades se han pronunciado sobre la modificación de la legislación

de las últimas en debatirlo ha sido la de la comunidad de castilla la mancha que se ha producido hace poco el debate además se produjo a instancias del grupo popular y fue aprobado de forma unánime

y que por ello es necesario ajustar su vida laboral a la situación real de desempeño además también como se ha dicho aquí esa posibilidad

social que recoge la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada

profesiones de naturaleza especialmente penosa tóxica peligrosa o insalubre o en los que se registren elevados índices de movilidad o mortalidad tal y como se pone de manifiesto en la iniciativa y se ha dicho hoy aquí para el establecimiento

y en este sentido diversas universidades han llevado a cabo estudios en relación con el colectivo de policías locales y policías autonómicos

en el desarrollo de la actividad por lo tanto no existe ninguna duda sobre que el desempeño de la profesión de policía local es un desempeño de una profesión de riesgo en los países de nuestro entorno y se ha dicho aquí se va en esta línea yo

en bélgica a partir de los cincuenta y cuatro en grecia a los cincuenta y cinco en irlanda del norte con treinta y cinco años de servicio en italia a los sesenta en noruega a los sesenta y en reino unido

y a sesenta los mandos por lo tanto vemos cómo es una tónica general que entre los cincuenta y cinco y los sesenta años en europa es la edad de jubilación

de los policías en general es verdad que aquí en el año dos mil nueve se llegó a un acuerdo y la ertzaintza pudo entrar en esa edad

podría haberse aprovechado para que también los policías locales pudieran entrar ahí pero no entró y por lo tanto de lo que se trata es de que se haga en este momento porque desde un punto de vista

la disposición adicional segunda de la ley cuarenta barra dos mil siete de medidas en materia de seguridad social modificaba la redacción y permitía establecer la redacción perdón del real decreto

y permitía interponer que los coeficientes reductores se aplicasen a otros colectivos a otras profesiones

y en aplicación de ese artículo pues podría entrar también la policía municipal porque es un agravio comparativo como decíamos que en este momento

aunque hoy aquí haya una unanimidad cuando se ha defendido este tema en algunos ayuntamientos

para el ayuntamiento o para la seguridad social la aplicación de estos costes reductores y la jubilación a los sesenta años pero en este sentido desde el grupo popular queremos decir

sobre el beneficio de la adopción de esta medida en el sentido de que el incremento del coste social derivado del adelanto de la edad de jubilación

y con el indudable impacto sobre las cifras de absentismo y periodos de incapacidad temporal

amén de mejorar su rendimiento y garantizar la prestación de un servicio en unas adecuadas condiciones psicofísicas que inciden por tanto en mejorar la seguridad por lo tanto como decía creemos que es una reivindicación de larga existencia que ha sido largamente demandada y sobre todo que es absolutamente justa que es necesario llevar a cabo

por mucho que el gobierno que en este momento está en españa sea del partido popular para pedirle

lo modifique y que por lo tanto sea considerada una profesión de riesgo y que pueda aplicarse

acabar como digo con una situación injusta y quiero finalizar diciendo que los policías locales y desde aquí lo quiero volver a remarcar deben tener el reconocimiento

pero también vamos a votar a favor de la enmienda transaccional nada más muchas gracias

el que hayan anunciado su voto afirmativo a esta iniciativa y felicitar al colectivo de policías locales

porque al fin y al cabo el acuerdo de hoy de esta cámara de este acuerdo son ustedes los protagonistas

un objetivo que es de justicia lo consigan para todas las policías locales de nuestro estado nada más muchas gracias eskerrik asko unzalu jauna

la brutal ofensiva de la organización terrorista del estado islámico cuyo objeto es la construcción de un califato en el mundo musulmán se centra en estos momentos

tras la primera guerra mundial en los estados de irak y de siria

arropado por turquía son abrumadoras las crueles masacres de civiles mujeres y niños

la mitad de ellos hacia kurdistán del sur la guerra que se está librando en irak y siria no es un enfrentamiento entre religiones ni un conflicto intercultural como pretenden proyectar los terroristas para reclutar

sino que constituye una batalla entre la civilización y la barbarie la comunidad internacional debería analizar

la atracción de jóvenes musulmanes de occidente hacia su integración en el estado islámico así como abordar las posibles vías de solución lehenengoa

kriminalarengandik segundo denunciar las agresiones del estado islámico en el kurdistán en general y especialmente contra la ciudad de kobané y exigir de la comunidad internacional la unidad de respuesta y la adopción de las medidas precisas para la eliminación de la violencia sectaria

en este sentido consideramos fundamental que todas las medidas se tomen en arreglo a las resoluciones de naciones

a la solicitud de la onu facilite el tránsito al kurdistán oeste besterik gabe gai zerrenda agortuta osoko bilkurari